muchas gracias señora presidenta esta moción que hemos presentado es consecuencia

el pleno pasado sino de la respuesta que nos dio el señor consejero de hacienda

nosotros preguntábamos sobre las medidas que pensaba adoptar el gobierno a la vista de que la recuperación del empleo en el país vasco iba a remolque del resto de españa el señor consejero de haciendo nos habló de que nos gastábamos mucho más dinero este año en la rgi nos habló de setenta y seis millónes de treinta y dos millónes más en gastos de educación lo digo porque como luego me dijo que no hablábamos de estas cosas

nos habló de que se gastaba cuarenta y ocho millónes de euros en gasto sanitario

cincuenta millónes de euros en la devolución de la paga extra de los funcionarios nuestras medidas evidentemente no eran

que ya lo sabemos ese debate ya lo tuvimos en el debate de presupuestos nosotros volvíamos a traer el debate de la inversión del gobierno de por qué este gobierno

no se aplica las medidas que les parecen bien y que exige a los demás y ponía el ejemplo de cómo el gobierno

cada semana cada quince días está con la matraca y el partido nacionalista vasco exigiendo

no solo ya no se retrasen sino que se aceleren y sin embargo aquí no se lo aplica el otro día comentaba yo cómo el señor lehendakari en el acto de la unión europea a cuenta del nuevo fondo de inversiones de europa decía que teníamos que remar todos en la misma dirección y nosotros le preguntábamos al señor consejero si pensaban coger algún remo de esa trainera para remar en la misma dirección y evidentemente que este gobierno invirtiera más como al final

a algunos les gusta enredarse con los datos con que si el picón que si que los datos no son ciertos los de la epa no son ciertos

y dejamos de hablar de datos es decir todos sabemos que la creación de empleo en el dos mil catorce en esta comunidad autónoma ha sido el peor de españa

vamos a dejar de hacernos trampas en el solitario y a ver si ponemos medidas para mejorar ese dato

para fomentar el empleo estable para mantener el que hay para incrementar el empleo

no volvamos a repetir el debate que ya tuvimos también en el debate de presupuestos el presupuesto de este año contemplaba menores inversiones reales del gobierno vasco que el presupuesto modificado del año dos mil catorce

no sobre lo ejecutado sobre presupuesto sobre presupuesto eran veinte millónes inferior y los dijimos en el debate de presupuestos y lo mantenemos ahora porque es así porque los números son del gobierno vasco nosotros no nos los inventamos cuando hablamos de ejecución de esas inversiones

a la hora de invertir a la hora de fomentar el empleo con esa inversión pública le falla algo y como ya estamos en el mes de marzo

los datos de este año la inversión que el gobierno de su presupuestos está ejecutando si nos vamos a las grandes partidas de inversión departamento por departamento

el fondo de investigación de treinta y cuatro millónes de euros con los últimos datos que nos ha enviado el gobierno vasco la ejecución es cero

si nos vamos a desarrollo económico de la dirección de tecnología y estrategia

investigación estratégica etcétera presupuesto ciento once millónes ejecución disposición de gastos cero si nos vamos

si nos vamos a medio ambiente nos vamos a ver las inversiones del gobierno vasco en las líneas del metro

vemos que la línea tres del metro la ejecución es cero cuarto y quinto la ejecución es cero el resto que son más de cincuenta millónes es cero

la disposición de gasto es cero si nos vamos a salud departamento de salud vemos la inversión prevista en cada uno de los hospitales

vemos que la ejecución es cero disposición de gasto cero vamos cuando digo ejecución digo disposición en gasto lo mismo si nos vamos a la formación profesional

es cero la inversión o si nos vamos a la reparación de los centros docentes la ejecución

es cero y podemos hablar de los centros de educación infantil presupuesto veintiuno millónes y la ejecución

es cero ahora bien alguien podría pensar que claro es que las inversiones

no se hacen a principio de año y entonces hay un problema de calendarios y por eso el gobierno vasco

al día en el que estamos la ejecución en las inversiones es cero pero sin embargo hay partidas

y que sí son de inversión por ejemplo la partida de la y

que tiene un presupuesto inicial de trescientos cincuenta millónes de euros la disposición de gasto a esta misma fecha es de doscientos cuarenta y seis millónes

las inversiones propias del gobierno vasco en sus competencias propias la ejecución a día de hoy es cero

que se financia desde el estado la ejecución es setenta y uno por ciento

o que el lehendakari nos diga en los actos organizados por la unión europea que

pero a la hora de la verdad lo que vemos y ya con independencia de la cuantía total del presupuesto de inversiones del gobierno vasco

eso no lo está haciendo el gobierno vasco y no lo está haciendo departamento por departamento

en ninguna de los capítulos inversores de inversión real

y no nos vengan otra vez a hablarnos de financiación de operaciones financieras que evidentemente nosotros no hablamos para nada de eso en la interpelación que hicimos y es una de las cosas con las que le gusta enredarse al señor consejero estamos hablando de inversiones reales capítulo sexto y séptimo ejecución del gobierno vasco líneas del metro cero

sarea cero en educación cero en sanidad digo las inversiones cero eso es lo que tenemos hoy ahora digo no me vengan diciendo que es que es el problema del decalaje y que toca en diciembre porque resulta que la y

en las mismas fechas con los mismos datos del gobierno y por lo tanto nosotros lo que hemos planteado es exigir ya de una vez que venga y que el gobierno vasco traiga un plan serio de inversiones de inversiones

un plan serio que diga cuánto se va a invertir cuándo se va a invertir cómo se va a ejecutar que cumpla sus propios presupuestos que cumpla sus propios compromisos

por lo menos los suyos y algo que es tan simple algo que es tan sencillo algo que todos los gobiernos tienen y plantean algo que al pnv algo que al lehendakari le parece muy bien y lo apoya cuando lo hacen los demás

si de verdad queremos modificar al alta incrementar las posibilidades de creación de empleo en esta comunidad autónoma lo lógico es que el gobierno vasco se sume también a

y por eso nosotros lo que hemos planteado y lo que hemos pedido y lo que le exigimos al gobierno vasco es que ya de una vez por todas nos traiga un plan de inversiones

pero de los compromisos del gobierno por lo menos que el gobierno cumpla esos compromisos ya que no los cumple hasta ahora por lo menos que se ponga las pilas si al gobierno vasco y al partido nacionalista vasco le parece bien la inversión porque genera empleo o por lo menos eso dicen ustedes cuando exigen a los demás o los demás lo plantean

ustedes y por lo tanto pedimos algo muy simple algo muy sencillo algo que es que este gobierno adopte
alguna medida real para fomentar la creación de empleo en la comunidad autónoma nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

señor damborenea nuestro grupo va a votar en contra de la moción presentada por usted no porque estemos en contra del espíritu de la iniciativa

sino porque entendemos que no tiene cabida en este momento presupuestario quiero recordarle que actualmente se está desarrollando en esta comunidad un plan de empleo

gracias en buena medida al impulso de nuestro partido porque fue el acuerdo que firmamos los socialistas en septiembre del dos mil trece con el partido nacionalista vasco y el gobierno para conseguir aquel acuerdo que se venía a llamar una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva

la estabilidad los recursos y gran parte de las ideas para elaborar un programa de reactivación del mercado laboral

el texto inicial de su iniciativa aunque después ha hablado usted de muchas más cosas y entendíamos que no podía ser de otro modo cuando el desempleo y la falta de expectativas de quienes lo sufren constituyen el principal problema del país

muchos de ellos jóvenes con excelente capacitación académica y muchos también personas mayores de cincuenta años que tienen enormes problemas para reincorporarse al mundo laboral

más diligente y más activo en la puesta en marcha de las distintas medidas incorporadas a ese plan que lo desarrollara con más energía con menos pachorra de lo que lo ha hecho

una actuación de choque como los planes comarcales para contratar desempleados de larga duración y de mayores de cuarenta y cinco años que estaban previstos ya desde septiembre

o que no se publicara hasta agosto la convocatoria del programa lehen aukera destinado a estimular que las empresas contraten en práctica a jóvenes titulados en paro o sin experiencia laboral previa el gobierno del señor urkullu tuvo que reconocer estos y otros retrasos e incumplimientos

una de las razones por las que decidimos facilitar la aprobación de los presupuestos de este año y quiero decirle que estamos muy vigilantes para que las actuaciones recogidas en el plan de empleo se desarrollen sin dilaciones indebidas y surtan sus efectos en la reactivación del mercado de trabajo

que compromete setecientos setenta y cinco millónes de recursos públicos y aspira a movilizar

eso es lo que se firmó en el plan los recursos pues están asignados los objetivos están fijados apoyar la financiación de las pymes

a los desempleados mayores y a la mujer que quiere incorporarse al mercado de trabajo impulsar la inversión productiva y el consumo generador de empleo a través de los planes renove mejorar la formación y capacitación de desempleados y activos y conseguir que el empleo que se cree sea de calidad esto es lo que los socialistas queremos y por lo que estamos velando porque el gobierno se ponga las pilas y lleve a cabo este programa

que la situación económica y social requiere y en cualquier caso quiero decirle que euskadi

lo que precisa es que se pongan todos los recursos previstos en el plan que se firmó el plan de reactivación del empleo al servicio de los objetivos marcados con la máxima diligencia para que sus resultados se hagan notar cuanto antes en sus destinatarios jóvenes parados mayores de cuarenta y cinco y personas con escasa cualificación profesional

detrás de los números es verdad hay personas pero para que esa afirmación no se quede en un sonsonete publicitario

con las herramientas que se han puesto en sus manos en este presupuesto nada más y muchas gracias eskerrik asko pastor jauna eh bildu taldearen ordezkaria zulaika andrea

egun on guztioi señor damborenea en la interpelación que le hizo

recordó y hoy lo ha vuelto a hacer las palabras

que formuló el lehendakari y la petición que nos hizo el lehendakari

entonces lo comentó la semana pasada en el pleno y hoy lo ha vuelto a hacer yo creo que hay un en cuanto a la preposición creo que en la interpretación que usted ha hecho de las palabras del lehendakari hay un matiz importante en la preposición que usted utiliza

los demás y parece que ustedes de un tiempo a esta parte entienden remar juntos con coger el remo y dar paladas a los demás

el matiz es considerable nos decía usted que

del estado mire en el estado los datos del cierre de febrero del desempleo

de cuatro millónes a cuatro millónes quinientos doce mil ciento cincuenta y tres parados una reducción de un cero coma treinta por ciento

lo que implica una reducción del cero coma setenta y cuatro por ciento la tendencia es distinta

ha repasado usted los datos de ejecución no se preocupe que el presupuesto se ejecutará se ejecutará las partidas de inversión a las que usted se ha referido y el resto de presupuesto también y decía que no le recordáramos que es lo qué estábamos haciendo

hablar de lo que efectivamente el gobierno vasco está haciendo en una materia tan importante como la de la reactivación económica y la generación de empleo

y así es señor danborenea empezamos a repuntar y no me cabe la menor duda de que usted se alegra de ello aunque por postureo político no pueda reconocerlo hemos pasado de la profunda a un discreto crecimiento y de la destrucción de empleo a una humilde recuperación de la contratación y del empleo orain beharrezkoa da

muchas gracias señora presidenta señor pastor

cada uno tiene los compromisos que tiene yo entiendo que ustedes han aprobado el presupuesto

dos mil catorce dos mil dieciséis que le tendré que decir a usted

la única en la que se incrementó el paro dos mil catorce a treinta y uno de diciembre entonces

los critiqué todos sobre todo porque todos venían con esa frase que decía se financiarán con la mayor recaudación

después de la lucha contra el fraude fiscal claro en qué ha consistido

en cero el presupuesto por este año se ha incrementado el cuatrocientos millónes

respecto al anterior de mayor recaudación dónde iban ni uno

de ningún tipo ni en inversión ni en no inversión de ningún tipo por lo tanto

cuál es su planteamiento desde luego nosotros lo tenemos claro nosotros por qué hemos traído esta propuesta por qué hicimos la interpelación porque vemos que vamos a remolque

no la que menos paro tiene sino la que más empleo cree

y lo explicó bastante bien el otro día el presidente de confebask

claro cada vez somos menos cada vez va a haber más jubilados con los mimos puestos de trabajo como la pirámide es así pues al final todos vamos a encontrar puestos de trabajo de los que queden claro

nosotros estimamos que además del pleno empleo en el país vasco necesitamos crear muchos más empleos

pero ustedes que son nacionalistas lo deberían de querer más que yo porque es la única forma de que fuera viable un supuesto estado vasco

lo que es inviable es con una pirámide así y sin crear impuestos de trabajo

eh bildu dice que le sorprende que el partido popular haga una propuesta sobre empleo estable no sé por qué les sorprende a usted mire la diferencia básica entre

también nosotros con aquellos y en gran particular como ahora todos son socialdemócratas o más de izquierdas pues la diferencia nuestra con todos es que para nosotros

el pleno empleo que la gente tenga un trabajo no que la gente tenga más subvenciones

esa es la diferencia a nosotros siempre nos ha parecido un mal dato incrementar la dotación para el paro o la dotación para la rgi porque eso lo que significa es que hay

esa es nuestra política social ya sé que nos diferenciamos del resto de la cámara pero la vamos a seguir defendiendo siempre porque además este no es un debate

es muy viejo este debate es muy viejo en el año noventa y tres y noventa y cuatro ya existía había que repartir el trabajo porque era imposible crear empleo ese era el debate que había en esta cámara y en el resto de españa y el partido popular dijo no no nosotros queremos ir hacía el pleno empleo oiga y no fue tan mal y en esta comunidad autónoma desde luego hubo pleno empleo ahora

nos dice usted que nosotros queremos incrementar los beneficios de algunas empresas

nosotros queremos que todas las empresas ganen dinero y que creen empleo

de todas las que crean en fin de todas las que no sean fantasmas

sí sí no hacemos diferenciación entre unas y otras

y nos dice usted que no quieren invertir en la y y que nos les importa el cemento y que ustedes las inversiones hay que

no los voy a repetir ejecución en investigación cero ejecución en no sé en las líneas del metro están a favor están en contra son medios no sé cero

eso es lo que llevamos a esta fecha de este gobierno claro y a la señora del se me acaba el tiempo me dice se ejecutarán

no es lo mismo crear empleo ahora que esperar a ver si en diciembre lo creamos porque

pero para nada es lo mismo nos dice que hemos pasado de la recesión al crecimiento claro como toda españa pero vamos también más lentos

ser los que menos paro tenemos nosotros queremos ser los que más empleo creemos a ver si nos entienden y las partidas previstas oiga

ejecución en ayuda a la conciliación es cero según esos mismos datos puestos a hablar ya de
amaitzen joan damborenea jauna voy terminando señora presidenta o que en las aes la ejecución es cero ya puestos a hablar de todo

febrero día doce consejo vasco de finanzas liquidación del fondo de inversiones estratégicas como nos sobran más de tres millónes de euros que no hemos invertido en dos mil catorce
nos los llevamos a las administraciones y no se invierte eskerrik asko damborenea jauna

mire señor damborenea nosotros entendemos que esto no es tanto una discusión de contabilidad o de finanzas como usted plantea

porque lo que sí es cierto es que este presupuesto tiene cuatrocientos cincuenta millónes más que el año anterior y a mí me da igual que esos billetes con una marca vayan destinados directamente así lo que yo quiero es que vayan al presupuesto general

es que haya fondos asignados para la creación de empleo especialmente de colectivos más desfavorecidos y esos son los setecientos setenta y cinco millónes que aparecen en el presupuesto

que se pueden movilizar del sector privado porque en cualquier caso quiero decirle otra cosa

sea el más legitimado para hablar aquí de creación de empleo y sobre todo de empleo de calidad y en todo caso usted decía el empleo que se crea en euskadi es como el que se crea en españa y el que se crea en españa como el que se crea en europa porque

de la crisis es toda europa y algo tiene que ver el señor draghi en este asunto bastante más que el señor rajoy bastante más porque además si quiere hablamos del empleo que se crea

y cuente como tres empleos empleo es que una teleoperadora que trabaja quince horas al mes y gana trescientos cincuenta euros desaparezca también de las listas del paro y aparezca como un nuevo trabajador ese es el empleo al que aspiramos ese es el empleo que garantiza una vida digna a los trabajadores de este país no eso maquilla las estadísticas pero nada más

eso no aporta cotizaciones a la seguridad social eso no soluciona el problema del déficit de caja de la seguridad social señor damborenea eso es engañar a la opinión pública

ese problema que son los desempleados desde luego no caen en ese engaño saben que no llegan a fin de mes que con cuatrocientos o quinientos euros difícilmente se puede hacer un proyecto de vida

ni se puede plantear un escenario de independencia de la vida familiar para los jóvenes ese no es el modelo de creación de empleo en el que creemos los socialistas

al que usted nos quiere dar como el horizonte maravilloso al que nos tenemos que encaminar pues sinceramente por ese camino nosotros no queremos ir eskerrik asko pastor jauna

exclusivos del pp la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario vasco el grupo parlamentario del pnv

en la economía social y de impulsar los créditos de formación certificables zelan izan daiteke eta zure mozioa gaurkoa enpleguari buruz da

insisto con la idea que le decía que creo que tienen un problemilla con esa preposición y lo deberían cambiar

coger el remo y dar paladas con los demás y no coger el remo para dar paladas

buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari señora consejera señorías presentamos desde el grupo popular esta moción

hace referencia a la situación singular que se ha producido se está produciendo

presentamos la moción porque la respuesta que la señora consejera dio a la interpelación que desde el grupo popular le planteamos fue nula a las cuestiones que le

bien podríamos decir señora consejera a la vista de la nula respuesta que vale usted más por lo que calla que por lo que cuenta pero

hemos llegado a un acuerdo importante y por lo tanto creo que recoge de alguna manera lo que planteábamos en la interpelación

una propuesta que no contemplaba el consenso participaba del consenso de las diputaciones y los ayuntamientos algo que nos parecía insólito que es una propuesta que

interfiere en las competencias de los ayuntamientos y las diputaciones que se puede interpretar que colisiona con otras leyes como la ley del suelo

contraste jurídico porque está plagada de imprecisiones desde nuestro punto de vista y por lo tanto nosotros presentamos la moción y el acuerdo que hemos llegado es el siguiente instamos al gobierno vasco a iniciar

teniendo en cuenta los retos actuales en los ámbitos

mediante un amplio proceso de participación ciudadana instamos al gobierno vasco a establecer los instrumentos de colaboración necesarios para que

se lleven a cabo en un marco de coordinación entre gobierno vasco diputaciones forales y ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca y en el seno de la comisión de ordenación del territorio del país vasco que respete las competencias que a cada ámbito institucional propias y que la propuesta de modificación de la cuantificación residencial y la fórmula asociada

y sigan conjuntamente el trámite que establece la ley de ordenación del territorio para su aprobación esto es lo que en resumidas cuentas le planteábamos a la señora consejera en la interpelación y yo creo que

conseguido llegar en el día de hoy es muy importante para retomar un trabajo importante que afecta a toda la ordenación del territorio y a la cuantificación residencial también que es una cuantificación que es vinculante aplicación directa y que tiene unos efectos importantes en el planeamiento de

que se vio alterado en la comisión de ordenación del dieciocho de febrero es muy importante y creo que

puede que esto se reconduzca con un fin mucho más participativo de mayor consenso respete las competencias de cada administración nada más agradecer a los grupos la disposición para llegar a este acuerdo yo creo que el gobierno y el grupo que representa al gobierno también ha hecho un esfuerzo importante y yo se lo quiero agradecer señor aldaiturriaga porque

no tengo ningún impedimento para hacerlo y creo que su labor también ha sido importante nada más muchas gracias eskerrik asko

alde eta mesederako irakurketan kokatu beharrean decía que hace dos años tuvimos un debate realmente un debate de calado sobre cuál era la posición de cada formación política sobre las directrices de ordenación del territorio y aunque el debate y el tema es árido son la herramienta

decidió crear para armonizar las políticas que afectaban e incidían de forma directa en el territorio y también decíamos hace dos años que esas políticas

de un modelo si se quiere incluso de convivencia porque hablábamos de todas las perspectivas que tenían que ser integradas a la hora de analizar y de revisar las políticas

tuvimos oportunidad hace dos años de hacer ese debate llegamos incluso a un acuerdo a un acuerdo mayoritario en esta cámara para que se iniciara ese proceso participativo para que se pusiera en marcha un proceso que contemplara todas esas dimensiones la medioambiental la social lo que afecta a las infraestructuras lo que afecta a la soberanía alimentaria o al desarrollo del tejido agropecuario etcétera y cuál es la realidad pasados dos años es que en ese terreno en ese terreno en concreto no se ha avanzado nada

o la herramienta y lo era aunque también lo décimos con sinceridad nuestra visión de lo que debieran ser las dot parece que difiere en bastante de lo que la mayoría de formaciones políticas entienden que tienen que ser las dot para nosotros se está apostando

la posibilidad de generar beneficio por encima de la sostenibilidad del medio y de un desarrollo endógeno de nuestro país pero en lugar de entrar a ese debate lo que hemos visto es que el proceso participativo se ha quedado en nada hoy y lo ha señalado

una iniciativa que vuelve a incidir en esa necesidad pero que incluye un nuevo elemento

en esos parámetros que acordamos en esta cámara no es menos cierto que lo que se ha hecho ha sido

en un caso en un caso porque parece que se está restando soberanía a los municipios a través de la aplicación de normativas o de un conjunto de medidas que limitan

de cada municipio para autorregular el uso de su propio suelo y de manera mucho más clara y definida con lo que tiene que ver con la llamada fórmula de cuantificación residencial

que se ha dado a conocer antes y también lo décimos con claridad la hemos firmado porque creemos que es necesario ese debate porque creemos que las diferencias son de calado y que probablemente ahí

y porque estamos radicalmente en contra de las formas de hacer política que residen en aprobar mediante decreto un treinta de junio una reforma de la fórmula de cuantificación residencial que lo que hace es dificultar la capacidad de desarrollo de los municipios y desatender la realidad propia de cada municipio para ser muy gráfico

estaba desfasada porque permitía construir más allá de lo que la demanda solicita la modificación que se ha planteado dificulta aún más a los municipios tener un desarrollo

el número de viviendas máximas que puede construir no es menos cierto que aumenta el nivel de exigencia mínimo que tiene que construir y eso es un error eso es un error porque es no atender a la realidad que estamos viviendo en la actualidad y es un error también plantear que

que los municipios adaptaran sus pgus a lo que esa ley establece en usos de suelo adquiera a través de esta modificación una prórroga de ocho años a que vuelvan a tener otros ocho años más para seguir manteniendo criterios de uso o de construcción para uso residencial que poco tienen

buscar solución a lo que era ya una medida de ocupación de suelo altamente peligrosa para generaciones venideras por tanto

las dificultades y las diferencias dificultades que esperamos poder discutirlas en un marco de colaboración no se si de acuerdo pero sí de coordinación entre las diferentes instituciones afectadas algo que hasta la fecha no ha podido ser posible pero que esperamos que a partir de ahora

egunon guztioi señorías nos encontramos ante una iniciativa que poco tiene que ver con la idea inicial de la parlamentaria que la promovió en la interpelación que da origen a esta moción se justificaba la iniciativa

que a su juicio estaba realizando el gobierno con motivo de la modificación en la fórmula para el cálculo de la cuantificación residencial fórmula que se viene aplicando por la comisión de

casi veinte años se hablaba y se sigue diciendo en la moción

de la usurpación de competencias forales y municipales en la materia de urbanismo cometidas en el expediente para la modificación de las dot

el texto de la moción contiene dos pretensiones que el procedimiento de revisión de las dot y en el seno de la comisión se respete las competencias de administraciones locales

que el respeto del gobierno a las competencias municipales en materia de urbanismo ha sido su norma de conducta en todos los años de aplicación de la ley del suelo y en cualquier caso los municipios son mayores de edad

muchos casos en que un ayuntamiento de la comunidad autónoma haya utilizado la vía del requerimiento de competencia contra el gobierno por entender que se produce esa invasión al que alude el grupo proponente

y que se incorpore esta a los trabajos de las directrices a este respecto señalar que este gobierno ya incluyó en su programa de trabajo la necesidad de revisar las directrices

iniciado por el anterior gobierno excepto en lo referente a la fórmula

y el tratamiento seguido respecto a esta dichosa fórmula es lo que motiva esta moción

como digo elaborada con un amplio consenso hace veinte años que ha estado orientada a un modelo que ha demostrado su eficacia pero que se entiende desfasada que necesita ser revisada adecuándolo a la realidad actual en materia demográfica

y necesidades reales de vivienda nueva de ahí que se proponga

más adecuada lo antes posible es una propuesta racional que pretende adecuar la fórmula de cálculo las previsiones de creación de vivienda nueva en los municipios teniendo en cuenta o de acuerdo a como decía antes la evolución de la población en los últimos años la variación del tamaño familiar

y el número de viviendas vacías o desocupadas existentes en los municipios

criterio de responsabilidad y sostenibilidad del territorio sin ocupar o artificializar innecesariamente más suelo que el preciso y señora lópez de ocariz no vulnera ninguna competencia foral ni municipal en su interpelación del pasado día veintisiete hacía referencia a los artículos ciento tres y ciento cinco de la ley del suelo

qué aspectos concretos de estos artículos resultan vulnerados por la actuación del gobierno

solamente a través de la prensa se ha transmitido que el gobierno usurpa competencias urbanísticas

en la comisión de ordenación del territorio se abordó el asunto de la cuantificación residencial y

sobre todo con los ayuntamientos para estudiar con más detalle la casuística de los efectos en cada uno de ellos creemos que todavía hay tiempo y espacio para el entendimiento y el acuerdo

se harán los esfuerzos necesarios para lograrlo y esto es precisamente

y que queremos poner en valor el entendimiento la colaboración y la lealtad interinstitucional así como el respeto al marco competencial y a la defensa de los intereses de los municipios en el proceso de revisión de las directrices del territorio

está ya recogido como decían en la transaccional todos estos elementos lo suscribiremos gustosamente desde luego no sin antes darle las gracias al señor lópez de ocariz por los elogios que me ha dedicado y merecidos a todas luces

una puntualización señor matute respecto a la fórmula que aparecía

hay que decir que ese decreto forma parte del inicio del expediente de modificación por tanto la fórmula que hace el gobierno no es definitivo y lo que hace es marcar la propuesta de salida del gobierno que sin duda en todo el proceso

el proceso que se siga para alcanzar un acuerdo se tendrá en cuenta como está ocurriendo en los últimos tiempos y es lo que recoge en la enmienda de transacción que hemos firmado y que sin duda desde este grupo trabajaremos

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señor consejero la modificación no sustancial

una cuestión de hace dos días esto viene desde el dos mil seis cuando el gobierno del lehendakari ibarretxe

gobierno en el cual también estaba la actual consejera que se nos ha ido parece que no le interesará tanto entonces era viceconsejera de ordenación del territorio modificación que fue continuada por el gobierno del lehendakari lópez y de la consejera unzalu

y por orden de la consejera de veinticuatro de febrero del dos mil doce se aprobó inicialmente la modificación

en este marco se celebraron tres talleres participativos como ustedes saben uno en cada territorio histórico y en este periodo de información pública se presentaron un buen número de alegaciones destacando por su carácter genérico las presentadas por los ayuntamientos gobernados por bildu y también las impulsadas por un grupo denominado desazkundea y los sindicatos lab ela y otras organizaciones sociales

del lehendakari lópez era un trabajo de diferentes gobiernos y contaba

número de participación y de iniciativa de las diferentes administraciones

en el que instaban al gobierno a suspender el procedimiento de modificación no sustancial

pero más sorpresa nos llevamos al ver que los posicionamientos de los partidos

hoy dos años después totalmente ha cambiado la señora lópez de ocariz portavoz del partido popular interpeló hace unas semanas a la señora consejera

argumentando la usurpación de competencias forales y municipales que conlleva

además planteaba que se estaba realizando dicha modificación como no sustancial cuando la antificación residencial es vinculante y no debería de realizarse a través de este procedimiento pero me parece sorprendente señora lópez de ocariz que usted diga que ese no debería ser el procedimiento

de la proposición no de ley de febrero del dos mil trece su compañero

se posicionó a favor de la enmienda a la totalidad del partido socialista que instaba a continuar con la modificación no sustancial y en ningún momento dijo que esa modificación usurpaba competencias ni forales ni locales

se ha planteado es evidente que nos parece más razonable la enmienda del partido socialista y es que se prosiga la modificación y la adecuación de las dot a los tiempos en los que vivimos y el partido popular

votó en contra de la enmienda transaccional alcanzada por bildu y pnv que solicitaba la suspensión de la modificación no sustancial por eso me sorprende que usted

sea la que plantee la suspensión y piden ustedes rigor cuando ustedes no lo tienen y señor aldaiturriaga usted tampoco usted le recuerdo la clase magistral que nos dijo en ese pleno que nos decía cuales eran las clases de modificaciones de las dot no estaba yo de parlamentario me he leído su intervención y usted decía

según el contenido de las alteraciones las siguiente cuatro clases de modificación revisión ordinaria revisión extraordinaria de remodificación sustancial o cualificada y modificación no sustancial o simple cuando no afecta a los elementos sustanciales y que tiene un carácter

usted decía es una incorrección importante que consiste en tramitar como una simple modificación puntual o concreta algo que se supone una modificación sustancial continuaba diciendo quiero llamar la atención sobre el hecho de que el expediente contiene varios aspectos

la modificación particularmente lo referido a la cuantificación residencial y ustedes ahora quieren tramitar como una modificación no sustancial

que era sustancial en definitiva han pasado dos años y parece que ustedes dos han cambiado los papeles aquel que decía que la modificación tenía que ser no sustancial ahora dice

y aquel que decía que era sustancial ahora dice que no lo es aclárense ya que ustedes piden rigor tengan un poquito de rigor ustedes también

lo es y seguimos defendiendo que la modificación

era el correcto modificación no sustancial correcto

a la totalidad que presentó hace dos años lo que hemos tenido que retirarla al ver

que no defendía la modificación y le daba una bofetada en toda la cara a la señora consejera cuando hace aquí dos semanas en la interpelación de la señora lópez de ocariz ella seguía y continuaba defendiendo la modificación y decía que era el procedimiento correcto

hemos tenido que retirar porque no va a ser el partido socialista desde la oposición quien tenga que defender cuando ni su partido la defiende por eso visto que también que la señora

se va a poner en marcha en verano de este año entendemos también

no vemos la urgencia como dice la señora lópez de ocariz de hacer esta modificación corriendo y deprisa si la revisión viene dentro de cuatro meses por lo tanto el posicionamiento que va a tener el partido socialista respecto a la enmienda transaccional que ustedes han alcanzado es que pediremos y lo recuerden ustedes para cuando votemos la votación por puntos votaremos a favor

y será una abstención en el tercer punto muchísimas gracias eskerrik asko zaballos jauna

usted sabe que este documento que se estaba tramitando y que ha sufrido muchas modificaciones y que no tienen nada que ver con el que se estaba tramitando el anterior gobierno

usted debe comparar lo que ustedes estaban tramitando y lo que se está tramitando nada que ver una cosa es la fórmula

qué es necesario una fórmula sí nunca hemos puesto en cuestión

sabrá que la diputación foral de álava se opuso

en el dos mil doce una alegación diciendo que no considera apropiado

el procedimiento de modificación no sustancial porque es un procedimiento

de la comunidad autónoma esa es la cuestión pero es que la fórmula tiene algunas cosas que no nos gustan pero es que documento va más allá de la fórmula este documento entra en la gestión urbanística señor aldaiturriaga porque la clasificación del suelo es potestad del urbanismo municipal tiene carácter de ordenación

en el planeamiento general nunca en las directrices de ordenación del territorio por lo tanto señor

con las competencias locales con las competencias de los ayuntamientos lo que no entendemos es por qué

el seno de la comisión de ordenación el consenso que esa comisión debe de llegar a alcanzar para tramitar estos asuntos

un documento que no cuenta con el aval ni de las diputaciones ni de los ayuntamientos

creo que más allá de que la fórmula nos guste o no lo que hay que llegar es a un consenso donde esa fórmula sea

entre todos por lo tanto creo que yo no he dicho ni he puesto en cuestión nunca la necesidad de modificar la fórmula

a esa modificación de fórmula este documento que se llevó a votar el dieciocho de febrero añadía muchas cosas más que nada tienen que ver con la fórmula

dos apreciaciones por orden de intervención señor zaballos el expediente de modificación de las directrices que inició el anterior gobierno socialista tenía muchas más cosas

tenía cuestiones que afectaban al modelo territorial que es mucho más amplio por eso el gobierno este gobierno tomó el acuerdo de

y sin embargo volver a retomar los trabajos referidos a la cuantificación residencial exclusivamente

está por tanto no se puede comparar no se puede decir que hay incoherencias sino todo lo contrario que el expediente de modificación puntual o normal de las directrices sigue su curso y que está en procesos de negociación en estos momentos con las administraciones

colectivos y público en general a la señora lópez de ocariz decirle que yo creo que en fin si algo

pero decirle que el gobierno vasco lo que no hace nunca en ningún caso es clasificar solo jamás es que no puedes usted lo ha dicho perfectamente es competencia de los municipios pero el gobierno vasco

el número de viviendas que en principio según el modelo territorial de los ptp le corresponde a cada municipio o sea el lugar exacto dónde va qué alturas tiene si crece hacia el norte sur este oeste

no puede entrar y no ha entrado en la vida

un poco por dejar las cosas claras que el gobierno vasco no clasifica es que no puede legalmente hacerlo solo los municipios por tanto yo creo que

decirle yo no digo nada en contra de la alegación que pudo realizar la diputación foral de álava en su momento lo único que le recuerdo es que su compañero el señor antón damborenea aquí presente hace dos años no dijo nada sobre lo que usted ha alegado no dijo nada que esta modificación no sustancial realizaba una usurpación de competencias a nivel local ni foral es lo que he dicho y eso es lo que hay

el párrafo de su intervención quiero llamar la atención sobre el hecho de que el expediente contiene varios aspectos también como digo

para calificar como sustancial la modificación particularmente hay dos uno el relativo al medio físico y otro el referido a la cuantificación residencial ustedes en la modificación que han planteado sí que han quitado cosas que planteábamos en la modificación del gobierno del lehendakari pero lo que quedan es la cuantificación residencial y usted aquí lo que dice es que se debería considerar sustancial esto es lo que decía hace dos años debería considerar sustancial porque contiene

y su modificación la que propone su gobierno es esa la cuantificación residencial por lo tanto no venga diciendo lo que valió

en el dos mil dos ahora como no le interesa pues no sé yo qué cuestiones pues es otra cosa diferente esto es lo que tiene los escritos

este año kutxabank ha ganado ciento cincuenta millónes y ha dedicado cuarenta y cinco a la obra social el año pasado fueron ciento ocho y veintisiete respectivamente en dos mil doce el primer año de funcionamiento conjunto

en total ha dedicado en estos tres años de existencia ciento veintiocho millónes de euros a la obra social si nos retrotraemos a los tiempos anteriores a la fusión

podemos darnos cuenta de que en el año dos mil once por ejemplo y ya estábamos en plena crisis es decir no es la época de vino y rosas de las burbujas inmobiliarias

solamente bbk ganó en el año dos mil once doscientos veinte millónes y dedicó ochenta y dos a la obra social en el año dos mil diez

en el año dos mil nueve doscientos ochenta y nueve millónes este año ciento cincuenta en el año dos mil ocho y esto sí que

en conjunto las tres cajas ganaron quinientos cincuenta y cinco millónes este año dos mil catorce como decía antes ciento cincuenta esto es importante porque en función de los beneficios se determina

que kutxabank destinan a la obra social se ha perdido desde que se dio la fusión

y los sueldos llevan congelados dos años el patrimonio neto consolidado de las tres cajas era el año anterior a la fusión de seis mil novecientos millónes de euros y en el año dos mil once se determina

entre el dos mil diez y el dos mil once hay un recálculo del patrimonio real de las cajas en el cual de determina que valen dos mil millónes menos de lo que se

y esto se hace de cara a la fusión queremos saber por qué se han dado estos datos queremos saber por qué hay un deterioro de los beneficios y de los recursos que kutxabank

dos mil once estábamos en una época de crisis pero queremos saber por qué la fusión de las tres cajas

determinar un mejor resultado económico y una mayor dotación a la obra social ha venido a suponer exactamente todo lo contrario menos beneficio menos obra social peores condiciones para los trabajadores y trabajadoras de las cajas y queremos saber también

que sucedieron antes durante y después del proceso de fusión y tiene una incidencia directa en estos resultados y en este descenso del servicio que kutxabank presenta a la sociedad gustatuko litzaiguke jakitea zehatz mehatz

bajaron la calificación de bbk en ese caso se habló de un desembolso en ese momento de ochocientos millónes de euros al poco o nada más hacerse cargo

en cajasur y queremos saber por qué se hizo esta operación y cuál es su balance económico nos da mucho que temer o nos hace temer que la operación se haya hecho con demasiada ligereza

según mario fernández en el año dos mil trece

entre los años dos mil trece y dos mil catorce en conjunto tenía que haber dado unos beneficios y eso lo dijo en el año dos mil once públicamente

en realidad han sido de dieciocho coma cuatro si hacemos caso a las cuentas que han presentado sobre cajasur

entre lo que pretendían ganar con cajasur y lo que en realidad han ganado claro

si digo que compro esta caja y que voy a ganar ciento ochenta millónes y luego gano dieciséis y nadie me pide cuentas y nadie me pregunta sobre qué cálculos he hecho esas previsiones pues bueno así es muy fácil tener fama de ser un buen financiero pero la realidad parece ser muy distinta

proyecto especulativo un gran pelotazo especulativo que se dio en barakaldo kutxabank o

hizo una potentísima inversión recompro los terrenos después de haber quebrado el proyecto inicial

muertos de asco unos terrenos que le costaron ciento dieciséis millónes de euros en barakaldo ciento dieciséis millónes de euros

en los dos últimos años alguien va a explicar con qué criterios se hizo primero el crédito y después la recompra de estos terrenos a un empresario que por cierto posteriormente fue

eta kutxanbanken cuánto dinero ha perdido kutxa en murcia

en las famosas operaciones en los complejos inmobiliarios de lujo en los campos de golf me parece que se distancia bastante de cuáles tienen que ser los proyectos que

con función social cuánto dinero ha perdido kutxa dónde está el balance dónde están las responsabilidades nadie pide cuentas de que se hayan perdido cientos de millónes de euros

a la función de esta caja nosotros creemos que sí que es este parlamento el que tiene que pedir cuentas primero los datos y en función de los datos reales pedir y exigir responsabilidades políticas incluso de otro tipo si las hubiera porque cómo estaba kutxa antes de las absorción recorde la semana pasada

político del partido popular dijo que la fusión de las cajas vascas para kutxa fue una especie de rescate encubierto cómo estaba kutxa que presentaba pérdidas en los dos años anteriores

en sus balances hasta que la auditora le llamo la atención y le exigió contabilizar correctamente determinadas partidas que habían sido maquilladas y efectivamente los dos últimos previos a la fusión kutxa la caja como decía también la semana pasada del territorio que mejor situación económica se encuentra de todo el estado español kutxa tenía pérdidas cómo han afectado

y podíamos seguir con este tipo de cuestiones pero es que cada una de ellas engloba cientos de millónes de posibles pérdidas entonces claro yo creo que en este país hay que acostumbrarse a exigir responsabilidades y una caja que tiene que cumplir con unos objetivos públicos y sociales

irresponsables tendrá que dar cuentas a alguien y hasta ahora esa dación de cuentas

a través de la creación de una comisión de investigación la aclaración completa de estas y de otras cuestiones porque si no estaríamos haciendo una dejación

permitiendo que el patrimonio que se debería gestionar con seriedad responsabilidad y rigor se gestione a la ligera con

a ser tiburones o lobos de wall street con el dinero de todos y todas por qué es kutxabank a día de hoy la entidad que más desahucios la comunidad autónoma vasca por qué ha realizado el veinte por ciento de los desahucios entre el año dos mil trece y dos mil catorce por qué una entidad con función social

qué es lo que pasa que desahucia por la mañana y por la tarde acoge a los desahuciados

en la cuestión de los desahucios y se les ha planteado se les ha planteado incluso cuando existían los órganos representativos de las cajas con propuestas concretas a las que han respondido que no

porque eso afectaría a la estabilidad financiera a la cuenta de resultados y que por eso no podían paralizar los desahucios por qué kutxabank sigue aplicando

y denunciada como tal por movimientos ciudadanos y también en los tribunales que supone un sobrecosto inasumible muchas veces para muchas familias por qué está malvendiendo

patrimonio inmobiliario incluso la inmobiliaria neinor que se ha vendido por unas necesidades urgentes de liquidez cuando una venta

podía haber generado mayores beneficios hau guztia jakin nahi dugu

lege ez idatzi bat la única ley no escrita que debería funcionar en kutxabank es la ley de la confianza la ley de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas que depositen en ellos

que confíen en kutxabank y que vean correspondida esa confianza

honesta seria y responsable esa es la única ley no escrita y esa es la ley no escrita que ha llevado a kutxabank a tener la posición que actualmente tiene en la sociedad vasca

hay que exigir efectivamente que esa confianza sea correspondida con unas prácticas acordes

con luz y taquígrafos en esta cámara eskerrik asko casanova jauna zuzenketarik

muchas gracias señora presidenta yo quizás igual pueda responder algunas de las múltiples preguntas que ha hecho el portavoz de bildu aquí en

dice a la ciudadanía vasca no pertenece a los accionistas y son tres que son las fundaciones

en el porcentaje que tiene en las acciones de kutxabank la función pública de kutxabank no no tiene función pública kutxabank

función pública tendrá el destino de los beneficios que las fundaciones que los accionistas decidan gastar en esa función pública u obra social y yo creo que estas cosas habría que tenerlas

un poco claras quien controla el banco

en este caso hay tres quien controla al accionista las fundaciones y aquí lo que no cabe hacer es decir que se hace una dejación de responsabilidades

alguien estima que han ocurrido unas cosas que le parecen mal o que no está de acuerdo y luego no asistir o no participar dejación de responsabilidades yo puedo estar de acuerdo con parte del discurso y de lo que ocurrió y cómo funcionó

quien tiene que exigir responsabilidades cómo y dónde pues antes en la caja de ahorros

la fundación pero claro lo que no puede plantearse entiendo yo vamos a ver cada uno puede plantear lo que quiera

aquí hoy es hablar de los beneficios de bbk en dos mil once y por qué hoy kutxabank tiene menos beneficios confundir primero beneficios con el reparto de los beneficios porque beneficios son más otra cosa es que parte de esos beneficios obligatoriamente

los beneficios no han sido ciento cincuenta millónes han sido más lo que pasa es que obligatoriamente

había esos beneficios en el año dos mil doce porque si miramos exactamente la kutxa como estaba de verdad y no cómo no sabemos como no estaba porque ni siquiera se presentaron las cuentas

quién tenía responsabilidad de eso los gestores quién se la tenía que exigir su accionista la caja de ahorros

ustedes allí pintan por qué no exigen allí las cosas por qué no participa eso es

la suya me habla del descenso de los beneficios y por qué se deben

que a ver qué queremos un banco que gane dinero y pueda repartir más beneficios o no porque es contradictorio que usted diga que se gana poco dinero y luego diga

usted que quiere más beneficios o menos porque los beneficios un banco todos sabemos como los obtiene prestando dinero y cobrando si no cobra pierde y si pierde

esto es así de claro en cualquier caso yo le voy a decir

está claro que a usted que lo ha mencionado el caso cabieces

de las cajas de ahorros cómo funcionaban lo mal que funcionaba alguna alguna operación que hizo otra y es evidente que no estamos hablando o no está planteando usted si hoy kutxabank está haciendo cosas raras o no hace cosas raras y por lo tanto yo
a lo que usted plantea pues es evidente que no podemos estar de acuerdo eskerrik asko damborenea jauna

tenía pensado empezar por lo que me había suscitado de interés político la iniciativa de bildu pero

que ha matizado el señor damborenea empezaré diciendo

decía bildu que a la sociedad usted decía que a los accionistas yo le digo que ni a la sociedad ni a los accionistas a los impositores

toda la sociedad propietarios cuando algunos ni conocen por donde se entra a las cajas o a kutxabank

presidentes de tres fundaciones convertidos en junta de accionistas sin haber invertido un solo euro

de kutxabank kutxabank es de sus impositores gracias a sus impositores

es posible que exista como banesto es de sus impositores en este caso de sus accionistas también o como otras entidades de banca privada o de banca

impositores y no exactamente en este caso de sus

después se planteaba si tiene una función pública

toda la banca tiene una función pública otra cosa es que se la pasen por el arco del triunfo

pero para que nació la banca cual es la función de la banca es una función social

de recoger depósitos de dinero para poder trasladarlos a la sociedad para poder prestarlos a particulares o a empresas y para que pueda fluir la economía

en si mismo cerrado simplemente al beneficio de sus accionistas que interés social

la banca en el conjunto de la sociedad la banca moderna

es una banca que tiene una función netamente social de ahí a que se cumpla va mucho trecho pero en cualquier caso es evidente que esto es así pero bueno

apreciaciones en realidad lo que me suscitaba de interés

bildu propone con su iniciativa que este parlamento acceda a la creación de una comisión de investigación con dos objetivos el primero es el de estudiar eventuales irregularidades

del proceso de fusión de las tres cajas de la redacción de esta iniciativa me sorprenden dos cosas la primera es lo ilimitado de la propuesta de estudiar

irregularidades su inconcreción si hay alguna razón para hacer algún tipo de investigación tendrá que ser sobre algún aspecto concreto no puede ser sobre algo

la indefinición de lo que busca entendiendo por vicisitud la sucesión de hechos positivos y negativos que ocurre en un tiempo determinado si como se aprecia en la iniciativa de lo que se trata es de abordar todo lo que acaecido en el tiempo de gobierno de mario fernández

por desproporcionado y por absurdo señorías estamos en un tiempo donde las comisiones de investigación parlamentaria ya nadie recuerda con qué fin se legislaron para qué objetivos están reglamentadas y cuál puede ser su interés para la sociedad a la que representamos tratando de abundar en este aspecto que me parece determinante para nuestra labor parlamentaria

expertos en derecho parlamentario cuando afirman que las comisiones de investigación tienen su encaje en la función de control parlamentario de la actividad del ejecutivo tienen una función fiscalizadora su constitución responde

en la actuación de un órgano gubernamental o administrativo

o deficiencias cuya responsabilidad corresponde al ejecutivo

y el objeto de las comisiones de investigación no es otro que el de averiguar

o ilegal haya tenido la actuación del órgano en cuestión comprobando la efectiva existencia de irregularidades por lo tanto se trata de comprobar la actividad del ejecutivo y confrontarla con el ordenamiento jurídico aclarar y evidenciar lo que haya acontecido

al caso que nos ocupa haciéndonos una serie de preguntas primera kutxabank es un órgano gubernamental segunda es un órgano administrativo tercera sus acciones y decisiones están bajo nuestras competencias políticas

los socialistas décimos que kutxabank rinde cuentas ante su consejo de administración ante sus impositores y ante sus clientes para ello cuenta con la junta general de accionistas con una comisión ejecutiva con una comisión de nombramientos una comisión de retribuciones una comisión de auditoría y cumplimiento y una comisión de control de riesgo

de las fundaciones además ante sus supuestos excesos abusos o irregularidades cuenta con los órganos supervisores con el banco de españa y con el banco central europeo y además y en última instancia

para enjuiciar y resolver esto no significa que una entidad financiera económica y social de la magnitud de kutxabank sea o deba ser ajena a la política a los socialistas nos interesa todo lo que acontece en kutxabank y como hemos manifestado

la última muy recientemente queremos que kutxabank siga

mayoritaria pública siga atendiendo a la economía local a las necesidades de la administración pública al tejido empresarial comercial rural de servicios del país vasco que mejore la circulación del crédito que mejore su rentabilidad que siga sosteniendo el empleo propio y que siga acudiendo a la acción social con una parte de sus beneficios sabemos que sobre todo estos objetivos señalados anteriormente vivimos un tiempo de incertidumbre

acabe en el lucro pero esto no se resuelve en comisiones de investigación esto se resuelve con ofertas políticas que mayoritariamente sean respaldadas por la ciudadanía

otra política del sector financiero público o semipúblico en euskadi en españa y en europa la estamos proponiendo y estamos trabajando porque llegue los socialistas pero

es evidente que hay valoraciones diferentes valoraciones positivas y negativas sobre la fusión pero esto es materia de la política de las correlaciones de fuerzas y no de las

en estos momentos en los que los reguladores miran con lupa a kutxabank y tratan de posicionarse sobre si la participación pública de las cajas en kutxabank se ajusta a la ley o hay que reducirla esta sobredisposición no beneficia a nada el interés público y social

del banco de españa un supuesto contrato irregular esa auditoría fue comunicada al banco central europeo

la fiscalía lo derivó a la justicia la justicia está actuando y los afectados próximamente deberán declarar y ya está todo en marcha

la investigación se desarrolla desde quien tiene competencias medios y experiencia ni el señor fernández ni el señor cabieces forman parte de la administración pública vasca no forman parte de ningún órgano ejecutivo bajo control de este parlamento

no están bajo fiscalización de este parlamento por todo ello solo nos queda pedir que la justicia actúe

y por supuesto votaremos en contra de la iniciativa de bildu eskerrik asko

en un programa de televisión de entrevistas a ciudadanos con líderes políticos se entrevistó al

y se le interpeló por las cláusulas trampa las cláusulas suelo

es que a mí también me ha pasado eso yo en una hipoteca que tengo me han aplicado una cláusula abusiva

iría a las diferentes entidades bancarias y contrataría la hipoteca con la entidad que le ofertara unas condiciones más beneficiosas en términos económicos pues yo no yo no hice eso y mucha gente no hizo eso mucha gente cuando tiene que pedir una hipoteca

a vital o iba a bbk vital o a la kutxa con los ojos cerrados porque era la caja del país y porque tenía confianza de que ahí no le iban a engañar y yo no soy enemigo de kutxabank

señor prieto yo también soy cliente de kutxabank

ahí es donde trabajo con kutxabank y no quiero que desaparezca al contrario yo ya le digo mucha gente va a pedir las cuentas o las hipotecas a kutxabank con los ojos cerrados hasta ahora porque había una confianza

ese es el problema que ha habido un deterioro de la imagen y no ha sido un deterioro de la imagen causado por una campaña de bildu

causado por las prácticas financieras de la propia kutxabank ese es el problema y ese es el quid de la cuestión cuando se planteaba que una decía el señor prieto es que toda la banca tiene una función social no la función de la banca es ganar dinero y punto no tiene ninguna función social

simplemente dinero y no solo tiene que revertir los beneficios a la sociedad a través de la obra social sino a través de la propia práctica financiera tiene que cumplir una función social porque sus dueños

bancarias pero esas fundaciones bancarias son herederas de las cajas de ahorros herederas jurídicas y herederas morales de las cajas de ahorro por tanto esas fundaciones bancarias tienen que exigir que su banco su banco cumpla con las funciones originarias para la que se crearon las cajas de ahorro sino quien está destruyendo las cajas de ahorros

que haya unas prácticas que no se correspondan en kutxabank con esa función pública y social

y no son eh bildu por eso le decía señora gorospe que eh bildu no tiene ningún interés en perjudicar el buen nombre de kutxabank al contrario

quien ha puesto un plan encima de la mesa para destruir el buen nombre de kutxabank para destruir el espíritu de las cajas de ahorros es hasta que de desmienta lo contrario y a tenor de lo aparecido en la prensa la propia directiva actual de kutxabank cuando presenta un plan

más banco menos caja reducir costes reducir salarios

sino en el conjunto de la plantilla y comportarse más como un banco

de hecho lo hemos repetido muchas veces lo que le ha hecho a kutxabank

que actualmente ostenta no es desahuciar más para mediante el terror conseguir que se le pague los créditos sino tener una identidad distinta

como sabían antes porque así era tenían una actividad financiera con sentido con tiento con medida con responsabilidad social y que de haber beneficios una buena parte de ellos iría a dotaciones y otra parte

a través de la obra social eso es lo que le ha dado la posición de liderazgo a kutxabank y no ser aplicar las teorías de la escuela de chicago que parece que aplica la banca de las dos escuelas de chicago de la de milton friedman y de la de al capone que parece que son las que aplican la banca al uso en el estado español

no es para deteriorar la imagen de kutxabank sino todo lo contrario

en el que se puede confiar y para que mantenga esa posición de liderazgo y para que preste servicios financieros en condiciones razonables y asumibles

para que no desahucie para que este país sepa que ahí cuenta con un instrumento porque son

y este parlamento no puede mirar a otro lado cuando ahí están pasando cosas como las que están pasando y una última puntualización ya que el tema daría para mucho pero sí señora gorospe

le instó a contabilizar doscientos millónes de una manera distinta y eso

hacer una nueva contabilidad en la que sí había pérdidas ahí están los datos y ahí están las indicaciones de la auditora

y le aseguro que no soy dueño del bbv para nada ni en un porcentaje chiquitín es decir esto de que es de los impositores los bancos pues no en todo caso de ser de alguien seria de los fundadores

la caja de ahorros municipal y la caja de ahorros provincial evidentemente otra cosa es que eso guste o no guste

yo creo que lo que está claro es que el debate que se traía era otro es decir irregularidades pues no sé la única que conocemos es la que está en el juzgado no se ha planteado ninguna más y vicisitudes del proceso de fusión

de los de cajasur porque cajasur ha dado beneficios desde el primer año otra cosa es que podía haber dado más o el señor fernández pensara que

pero cuando nosotros planteamos y hablamos del modelo que se quiere el modelo que se quiere

que cuando tú tienes una cuota de mercado en un sitio cercano al cincuenta por ciento o superior y todos los demás compiten y tú no compites con ellos fuera

si además hay que hacer todo lo que usted plantea pues es muy probable que entre en pérdidas en poco tiempo

fue lo que nosotros hemos planteado desde el principio pero fíjese usted

y a la vital les hubiera interesado primero que le intervenga el banco de españa y luego comprarla como cajasur pero entonces ya no hablaríamos de la ciudadanía vasca como dueña

cómo es posible como usted dice que si una da pérdidas y otras dan beneficios a la hora de valorarlos y repartir las acciones del banco

esa es la única vicisitud y las conocemos todos hace ya mucho tiempo sí

a renegociar eso claro

no sé si estarían dispuestos a renegociar eso cuando me habla de desahucios

antes de que llegara usted y yo me molesté en mirar en los años de la crisis año por año a ver qué entidades

tenido aquí y están los datos en este parlamento y no era kutxabank como usted ha dicho la que más desahucios ha producido en estos años de la crisis pero ni de lejos

pues que una de las que más había desahuciado era caja laboral como ese dato era objetivo era así y otra para su sorpresa quizás para la mía y para la de cualquiera pues eran el banco de santander

y por qué porque si usted mira cómo la caixa de repente es una de las entidades que más créditos concede en el país vasco

comiendo cuota de mercado a kutxabank y por qué la caixa puede desahuciar más que otros porque da más créditos y por qué van donde la caixa a que les den créditos pues porque a lo mejor los hace más competitivos no lo sé yo sé una cosa

que por mucho que usted se empeñe en pensar que kutxabank lidera hasta los desahucios pues no

ser muy solvente señora gorospe a decir que se encabeza el ranking de beneficios porque una cosa es ser el ranking de solvente y otra el ranking de beneficios y el ranking de beneficios ojalá pero por desgracia tampoco lo encabezamos

usted la pregunta porque la he formulado no se la he formulado a usted directamente y claramente baina

hortik ateratakoak ha sufrido un deterioro de imagen behin baino sarritan esan dugu ez

kutxabank cuenta con la confianza de la gente zuek esaten zenuten

ez duzue lortzen no tiene ese deterioro de la imagen que ustedes dicen

de su tesón en esas campañas de desprestigio

efectivamente se puede tener beneficio hombre un banco

ustedes están haciendo que euskadi que kutxabank que el gobierno que este parlamento que son vehículos que circulan a buena velocidad

y destinando todo su esfuerzo señor casanova a poner palos en la rueda para que parezca que es un vehículo que circula con el freno de mano echado

gracias presidenta es un tanto desconcertante y sorprendente que no hay nadie del gobierno

de temas que le conciernen directamente como es este asunto pero en fin ellos sabrán a lo que se quieren dedicar

se mide en la rapidez y claridad con la que contesta a las peticiones de información que le incomodan

de la oposición la transparencia que se limita a difundir solo aquello que le viene bien al ejecutivo no es tal transparencia es publicidad propaganda o autobombo como se quiera denominar la que trae hoy mi grupo a esta cámara tiene que ver con la primera acepción de lo que se entiende por transparencia en la gestión pública pero también hablaré un poquito de la segunda como saben hasta ahora el gobierno

a demanda de los grupos parlamentarios información de los contratos menores que realizaban los distintos departamentos del ejecutivo y los entes dependientes de ellos es decir de aquellas adjudicaciones de bienes o servicios por un importe inferior

en el caso de la administración general y de menos de cincuenta mil en el caso de empresas

es una información que nos parece importante para hacer un seguimiento y control del uso que el ejecutivo hace de esta figura administrativa donde la discrecionalidad del gobierno es mayor donde se pueden dar irregularidad como el fraccionamiento del contrato o las adjudicaciones clientelares

quiero recordar que una de las razones para establecer estos informes trimestrales fue controlar

y deban hacerse por el personal de la administración algo en lo que los sindicatos

han puesto el acento en numerosas ocasiones de ahí la conveniencia de que los parlamentarios pudieran tener un conocimiento puntual a los mismos para poder cumplir sus tareas de seguimiento

de hecho de esta manera y gracias a esta práctica de envíos trimestrales fue como nos enteramos de la compra de informaciones en medios del grupo noticias

por parte de distintos departamentos del gobierno un asunto inaudito de enorme gravedad que está en los juzgados y que desde luego sigue vivo políticamente

que el resto de los grupos de la oposición se han encontrado exactamente con el mismo obstáculo

del pasado año concretamente ante la petición que había hecho el grupo socialista del informe

al tercer trimestre del dos mil catorce el consejero de función pública hoy ausente señor erkoreka nos respondió con una enrevesada negativa porque se limitaba a comunicar burocráticamente que el veintinueve de abril de dos mil catorce el consejo de gobierno

instrucciones sobre buenas prácticas en la celebración de contratos de servicios ese era el curioso nombre que tenía el artículo en cuestión y que el apartado trece punto tres curiosamente referido a informes

anual la viceconsejería competente en materia de función pública emitirá un informe sobre los contratos celebrados dicho informe se remitirá a las direcciones de servicios

lo que el señor erkoreka nos venía a decir ocultándolo en parte que lo que antes se podía conocer cada tres meses a partir de este momento se conocería a año vencido es decir se ofrecerá la información

y en el momento en el que el consejo de gobierno tenga a bien dar el visto bueno al informe mencionado por cierto a fecha de hoy doce de marzo del dos mil quince todavía estamos esperando el informe del dos mil catorce

la comunicación del señor erkoreka porque lo hemos pedido y no tenemos noticia alguna sobre el mismo es cierto que a raíz de la denuncia pública que hicimos de este intento

eso sí sin que se note ha comenzado a publicar esas adjudicaciones en el registro de contratos del sector público vasco y algunos de los departamentos no todos nos han sorprendido recientemente facilitando los datos que hace unos meses nos negaron

absolutamente nada sin embargo aquí estamos hablando de transparencia

no de la información que se da a desgana o se arranca de mala manera como si fuera una muela dañada para nosotros y supongo que para el resto de los grupos de la oposición

dificultar entorpecer hacer más difícil la labor de control del parlamento sobre sus actuaciones porque otra explicación o razón no parece razonable que exista

por cada uno de los departamentos no es lo mismo que hacerlo cada tres meses digerir y procesar los contratos de todo un año presentados en bloque es como mínimo bastante laborioso y difícil sobre todo cuando se entrega esa memoria el siguiente año está ya iniciado como es el caso que nos ocupa terminando el primer trimestre del dos mil quince

eso parece que no se le escapa a nadie y menos al gobierno que para eso metió ese punto expresamente en el informe anual en la nueva normativa sobre contrataciones a nosotros nos parece que esto es claramente un intento de cerrojazo no se nos ocurre otro calificativo

aquí porque nos parece que es un desprecio y un insulto a este parlamento y también al sentido común cuando mayor es la demanda de transparencia y rendición de cuentas que existe en la sociedad

que realiza y además lo hace de forma zafia y en total contradicción eso sí con el discurso que nos hace de cara a la galería porque

lo que se predica es por eso que lo que nosotros planteamos en esta cámara reclama del gobierno una rectificación y me alegra comprobar que esta petición ha encontrado la sintonía de los grupos de la oposición en esta cámara con los que sinceramente decir que no hemos tenido excesiva dificultad

porque de eso estamos hablando de principios como la transparencia la rendición de cuentas y el control parlamentario algo a lo que se dedica fundamentalmente este parlamento principios a los que un gobierno democrático que se precie no debiera poner obstáculos todo lo contrario

en que esto no ocurra y este gobierno el que preside el señor urkullu
entorpecer la labor de este parlamento y esperamos que hoy aproveche esta oportunidad para rectificar muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

ez da posiblea miren la transparencia no es una moda no es algo que hace bonito de cara a la ciudadanía

los parlamentarios y parlamentarias debemos tener las herramientas y la información necesaria para realizar nuestro trabajo y eso es lo que venimos a pedir hoy que se envíe a esta cámara trimestralmente la información sobre los contratos menores

izan dezakeela sabemos somos conocedores de que por medio de preguntas parlamentarias

detalles correspondientes a los contratos públicos que consideremos pero no se trata de eso se trata de dar un paso más se trata de que el gobierno de oficio

y la administración se ha modernizado y creemos que también tenemos que modernizar la relación entre el gobierno y el parlamento si el gobierno realmente en la transparencia y en la publicidad activa de la información aquí aquí tiene una oportunidad inmejorable para ponerlo en práctica bitxia da bitxia da benetan

guztioi también lamentar no poder saludar a ningún miembro del gobierno en este tipo de debates que a buena cuenta seguro que

muy brevemente porque hay debates que parece que son muy sencillos de resolver parece a priori que son muy sencillos de resolver y yo creo que uno este es uno de ellos a nadie se le escapa que vivimos

especialmente necesitados de proyectar de cara a la opinión pública algo más que una imagen

que le digan al ciudadano que pueden confiar en sus administraciones públicas que pueden confiar en sus instituciones

públicas como administración y como políticos hemos entendido realmente el grado de desafección de enfado y de distancia en cualquier caso de desconfianza también que los ciudadanos tienen ante la administración pública y que

no en vano los gobiernos los parlamentos este también este gobierno y este parlamento va a debatir en breve una ley que entiende o que quiere o que pretende corregir esa desafección esa distancia

medidas de este tipo la ley diecinueve barra dos mil trece conocida como ley de transparencia impulsada por el gobierno del partido popular

habla expresamente en el capítulo en el que llama publicidad activa en concreto

hace una referencia expresa a la necesidad o a la idoneidad de publicar trimestralmente con carácter trimestral contratos menores pero

en este parlamento también en su artículo ochenta y ocho hace una referencia similar prácticamente calcada a la de la ley de transparencia nacional tiene carácter básico hace una referencia expresa también a esos tres meses

mejora de la administración pública intentar recuperar la confianza perdida del ciudadano en el ejercicio de la política y en la administración

todo correcto por tanto no se entiende esta norma del gobierno vasco

en transparencia objetivamente se retrocede es verdad que todo o casi todo tiene una explicación es verdad que todo o casi todo se puede explicar

del por qué este retroceso por parte del gobierno vasco en una práctica que hasta ahora funcionaba de una manera correcta tan correcta tan correctamente funcionaba

en concreto a la hora de adjudicar a través de contratos menores determinados

y es verdad que después de la iniciativa presentada por el partido socialista se ha vuelto a medio cambiar

se cambió definitivamente la pregunta la pregunta que creo que deberíamos de ser capaces de responder hoy es por qué otra pregunta que creo que deberíamos ser capaces de responder hoy es si es necesario si es necesario

en esa práctica de transparencia y si es necesario que se produzcan estos debates en un momento en el que deberían de ser debates superados superados que a estas alturas estemos con este tipo de debates llama poderosamente la atención

sino por responsabilidad del gobierno vasco nosotros

de ámbito nacional es una ley útil y eficaz creemos que el proyecto de ley

es útil y necesario y creemos que en cualquiera de los casos siendo benevolentes es un profundo error este cambio de actitud del gobierno vasco a la hora de remitir con carácter trimestral a este parlamento información sensible

para la acción de la oposición votaremos a favor de la enmienda transada entre el partido socialista y eh bildu

una rectificación urgente inmediata por parte del gobierno vasco porque y perdonen por este espacio común o este lugar común además de serlo hay que parecerlo aquí nadie

pero no permitamos que la sospecha crezca o que la duda anide en nuestros corazones muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

y estamos ante el más claro ejemplo de la tal manida frase periodística que dice que

pero en este caso aplicado a la política también podríamos aplicar en este caso

en la administración vasca y de cambiar profundamente el régimen de acceso a esa información tanto para los parlamentarios como para el conjunto de la ciudadanía se está refiriendo

por el que se aprueban las instrucciones a las que nos referíamos antes y cita que el punto trece punto tres de esas instrucciones se establece

sobre los contratos celebrados en lugar de informar trimestralmente como se venía haciendo a solicitud de los grupos parlamentarios

que se cambia sí pero se cambia a mejor usted afirmó que tuvieron que bucear

no sabemos si por falta de oxigeno de tanto bucear o porque tanta presión submarina les provocó algún barotraumatismo que les obligó abandonar la inmersión

del acuerdo en su punto segundo que literalmente dice lo siguiente los contratos de servicios celebrados por la administración general y las entidades de la administración institucional deberán ser inscritos en el registro público de contratos para su publicidad y conocimiento

todos los contratos se van a tener que publicar en el registro vasco de contratos todo significa que también se publicarán los contratos menores

por lo tanto este gobierno está publicando en la web del registro vasco de contratos toda la información que antes estaba disponible en el perfil de contratante pero además

por lo tanto todas esas acusaciones suyas todo eso que decía de que este gobierno ha dado cerrojazo al acceso por parte del parlamento a los contratos menores

no nos parece correcto hablar de cerrojazo a la información

habilitar una página on line donde cualquier persona parlamentario o no parlamentario pueda

hay que meterse en la página del registro vasco de contratos y más que bucear

en el buscador habilitado para ello gobernu honek ez du inoiz kontratuei buruzko informaziorik ezkutatu

de hecho su grupo lo solicitó en numerosas ocasiones y no solo trimestralmente

pero es que además antes tampoco se enviaba una relación completa de todos los contratos por qué

ya existía la obligación de publicar los contratos que no fueran menores

le pongo como ejemplo la contestación del lehendakari a la solicitud de información documentada de idoia mendia sobre la contratación de lehendakaritza

dos mil trece en la respuesta el gobierno le facilita la relación

pero le señala que el resto de los contratos están publicados en el perfil del contratante y eso era lo mismo que se había venido haciendo con este tipo de solicitudes siempre también con el gobierno anterior ahora en cambio

es decir se pueden consultar todos los contratos en el registro vasco de contratos por lo que no podemos entender ese empecinamiento en que el gobierno tenga que seguir enviando cada tres meses un informe a la cámara cuando cualquiera de nosotros

actualizada y al instante y no solo cada tres meses

es por esa razón que ante la solicitud de información de la parlamentaria gloria sánchez en relación con la contratación de lehendakaritza

ahora sí dos mil catorce la respuesta es que toda esa información es pública y se puede consultar en la página web del registro vasco de contratos e incluso se le adjunta el link de la propia página se lo decía al principio de mi intervención se están

parece que a algunos les molesta que este gobierno esté dando pasos reales en la implantación y desarrollo de políticas que favorezcan el acceso a la información pública

en materia de contratación administrativa la ley estatal de transparencia

que la publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente que es también lo que se ha recogido en el proyecto de ley de administración pública pero aquí el gobierno este gobierno vasco

incluso ha ido más allá de las obligaciones que impone la ley de transparencia y el propio proyecto de ley porque ya disponemos al alcance de cualquiera de toda la información sobre los contratos menores sin necesidad de tener que esperar a ningún informe por lo tanto

cuando habla de que el informe de externalizaciones pasa a ser trimestral a anual y afirma que eso vaya a dificultar el acceso a la información sobre contratos menores

a conocer esa información a año vencido no es cierto la información está disponible en cualquier momento

ahora lo puede conocer en cualquier momento y desde donde quiera sin tener que esperar al informe al que usted aludía lo único que hace falta es

y meterse en la página web del registro para teclear los contratos que cada cual desee buscar

para realizar la búsqueda por nuestra cuenta horregatik guztiagatik garrantzi handia ematen diogulako gai honi